gracias presidenta buenas tardes a todas y a todos señor lehendakari señores miembros del gobierno vasco creo que no se trata en fin tanto de analizar lo que usted señor lehendakari ha dicho a lo largo de la mañana de hoy

como sobre todo de analizar cuáles han sido los resultados de sus políticas durante estos tres años de legislatura es decir qué es lo que sus políticas han determinado en relación a los asuntos que importan a la ciudadanía vasca es decir analizar cómo estaba euskadi en el año dos mil doce

a día de hoy cómo estaban los ciudadanos vascos en el año dos mil doce y cómo están los ciudadanos vascos a día de hoy en concreto y evidentemente cómo lo están pasando en fin el común de los ciudadanos vascos que ha atravesado

tan brutal se trata por lo tanto de hacer un balance serio y riguroso de lo que ha hecho este gobierno el gobierno no puede ser un mero notario

las cosas que han ido evolucionando sino que explique cuáles han sido las propuestas que ha puesto encima de la mesa que ha articulado y qué es lo que ha provocado de la sociedad vasca y analizado todo ello es obvio en nuestra opinión que ustedes han fracasado es obvio en nuestra opinión que tenemos un gobierno

y un lehendakari perfectamente prescindible y seguramente lo peor de todo esto sea la insensibilidad que hoy ha vuelto a demostrar durante su intervención creo que eso es lo que más

y lo que nos parece más grave teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran miles de ciudadanos vascos por lo tanto un gobierno inactivo incapaz e insensible por un lado ustedes no han impulsado ni una sola de las reformas modernizadoras que euskadi necesita ni una sola de ellas

no han solucionado los principales problemas de los ciudadanos vascos en todo este tiempo se ha incrementado la precariedad laboral la pobreza y la desigualdad y aunque determinados datos económicos pueden ser considerados como positivos

en determinados datos económicos lo cierto es que ello no se ha traducido ni se está traduciendo en creación de empleo estable y de calidad ni tampoco en mejora

por tanto tenemos un gobierno que no impulsa las reformas que euskadi necesita y que se mantiene de brazos cruzados se ha mantenido de brazos cruzados en relación como por ejemplo al entramado institucional vasco a la reforma de la ley de territorios históricos que debatiremos en breve a consecuencia de una iniciativa planteada por el grupo socialista o en relación

todo ello en todo ello no ha puesto ningún tipo de interés el actual gobierno vasco no ha impulsado ni una sola medida reformadora tenemos un gobierno

los datos económicos y sociales así lo demuestran un gobierno vasco además que indigna a las víctimas del terrorismo y que fomenta la teoría del conflicto político

rueda de prensa dada por el portavoz de este gobierno por lo tanto un gobierno inerte inactivo incapaz e insensible gobernu bizigabea

bien solos o bien acompañados y para qué

su acuerdo con el grupo socialista con el partido socialista para repartirse quizás el tribunal vasco de cuentas públicas para repartirse determinados

para nada más no ha habido ningún cambio relevante a mejor durante estos tres años

al menos en relación a la economía a la marcha de la economía nos ha citado una serie de iniciativas que ustedes han

tres años de legislatura cuáles son los resultados

cuál es la incidencia real que han tenido en el bienestar de la sociedad vasca qué logros han obtenido en relación a la creación de empleo empleo estable y de calidad en fin en relación a la precariedad laboral en relación a la pobreza o en relación a la desigualdad puede usted darnos algunos datos concisos en relación a esta cuestión qué

nosotros pensamos que no han obtenido ningún resultado provechoso las cosas siguen básicamente igual y muchos ciudadanos vascos a día de hoy están peor que como estaban

veamos algunos datos datos que interpelan a su gobierno y que les deberían preocupar según la encuesta de necesidades sociales de dos mil catorce más de ciento sesenta mil vascos sufrieron problemas de alimentación graves o muy graves y de estos

sintieron la sensación de hambre durante el año pasado según la encuesta de la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social más cien mil vascos se encuentran en una situación de pobreza severa cifra que ha crecido

desde dos mil nueve además una de cada cuatro personas no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos

una semana al año en euskadi entre dos mil doce y dos mil catorce las situaciones de pobreza entre menores de catorce años ha avanzado a mayor ritmo que en el resto de la población la tasa de pobreza de menores de catorce años aumentó siete coma tres por ciento en dos mil ocho a nueve coma cinco por ciento en dos mil doce y a once coma dos por ciento en bi mila hamalau estos son datos reales que a usted le debería preocupar

empleos a jornada completa durante la crisis cada vez hay más trabajadores a jornada parcial y menos trabajadores completa y siguen bajando los salarios y surge también en euskadi una nueva clase social

llegar a final de mes cuatro de cada diez nuevos contratos firmados en euskadi son

desde dos mil ocho la parcialidad se ha incrementado en doce puntos del veintisiete al treinta y nueve por ciento y también se ha incrementado en el último año del treinta y ocho a casi el cuarenta por ciento el once coma cinco por ciento de hogares de euskadi tiene dificultades para llegar

el treinta y cinco por ciento de los hogares monoparentales de euskadi no tienen satisfechas sus necesidades básicas según encuesta del gobierno vasco estos son datos absolutamente reales el ces señala el aumento también de la pobreza

la encuesta de pobreza y desigualdad del gobierno vasco refleja que en dos mil catorce un once por ciento de la población vasca declaró dificultades para mantener la temperatura adecuada en el hogar lo que supone más de doscientos treinta y siete mil personas

de más del treinta por ciento respecto a la encuesta de dos mil doce y de hasta un ciento setenta por ciento sobre las cifras de antes de la crisis y esto es responsabilidad

resolver estos problemas y sin embargo no lo hace la mayoría de trabajadores que pierden su empleo se perpetúa en el paro el setenta por ciento de los desempleados

tienen a todos sus miembros en paro qué tiene que decir

señor lehendakari qué es lo que ha hecho durante estos tres años para resolver estas cuestiones la vasca es la comunidad autónoma donde más ha bajado la satisfacción en el empleo y podemos hablar también del éxodo juvenil casi

menores de treinta años han abandonado euskadi en los últimos cinco años el crecimiento económico no se traduce en empleo aumenta la precariedad y aumenta la desigualdad en el reparto de la riqueza más de la mitad de los nuevos contratos dura un mes o menos y además

se frena en euskadi mientras la deuda de la administración se mantiene en volúmenes absolutamente elevados usted percibe estos problemas los tiene en cuenta si no ha sido capaz de resolverlos hasta ahora cómo va a pretender resolverlos a partir de ahora con las mismas recetas únicamente echando la culpa

mantenemos en euskadi altos niveles de paro precariedad laboral pobreza infantil

día a día a día de hoy hay más desigualdad que hace un año que hace dos y que hace tres y usted no ha tomado ninguna medida para acabar situación para resolver en definitiva los problemas de la gente langabezia prekarietatea pobrezia eta

dauden euskadin hauek dira gobernu honek konpondu behar dituen arazoak por lo tanto fracaso absoluto en lo que se refiere a la materia económica nos dirá que estamos mejor que en otros lugares de españa pero eso ya era así antes de que usted llegara a este gobierno

menos mejor que en otras partes de españa en relación al pasado en relación

dice usted que contribuyamos al final de la violencia si ustedes quieren contribuir

lo que tienen que hacer en primer lugar supongo que será celebrar las detenciones de miembros en lugar de criticar esas detenciones como algún miembro de su partido político

ha dicho en las últimas horas en lugar de criticar las detenciones de miembros de eta puesto que usted dice que pretende

lo primero que debería hacer es decir que efectivamente esa es la línea que hay que seguir deteniendo a miembros de eta desde luego la solución no puede ser una especie de campamento de verano compartido entre víctimas y victimarios sino defender el estado de derecho

atender como merecen las víctimas del terrorismo promover la justicia la memoria y la verdad de los hechos ocurridos eso es lo que tiene que hacer usted y deslegitimar

la teoría del conflicto político porque precisamente es esto lo que ustedes han hecho durante todo este tiempo y en concreto lo que han venido haciendo durante las últimas semanas en esa reunión de alcaldes que usted convocó esa pretensión de

para proponerles la realización de homenajes a las víctimas del terrorismo

en fin uno de los partidos políticos que más ha sufrido la violencia terrorista en euskadi no ve que esto es absolutamente inaceptable que si quiere acabar con el terrorismo

que han sido atacados durante años por eta en fin es un insulto por lo tanto

y una propuesta hecha con muy mala idea y una falta de respeto absolutamente inaceptable veamos el listado de homenajeables que usted entregó

introducir en esa lista a personas en fin a etarras fallecidos en operativos policiales aunque los casos hayan sido investigados y archivados por la justicia le parece normal incluir en esa lista a personas cuya muerte fue responsabilizada

y a causas naturales por ibarretxe o juan mari atutxa le parece normal incluir en esa lista a personas fallecidas por vehículos particulares le parece normal incluir incluso casos de suicidios y media docena de fallecidos por afecciones cardíacas de cáncer o de otras dolencias estos son los hechos que ustedes han promovido durante todos estos años y en concreto durante las últimas semanas

los conoceréis lo cierto es que el listado de víctimas dignas de ser homenajeadas que ha elaborado su gobierno que ha elaborado usted no solo ignora sino que oculta resoluciones de la justicia española de la francesa de la mejicana

gatazka politikoaren teoria bultzatzeko zalantzarik gabe semejante proceder no hace sino dar oxigeno a quienes todavía aspiran a hacer valer la teoría

jonan fernández hace lo que ya hizo en lokarri y en elkarri pero ahora el responsable es usted señor lehendakari por ponerle sueldo público y despacho y por mantenerlo

de todas estas medidas que están impulsando durante los últimos años y en concreto durante las últimas semanas efectivamente queda mucho por hacer en lo que tiene que ver la convivencia y la derrota de eta este verano hemos sufrido pancartas con anagramas de eta

a etarras ataques a cajeros automáticos y al propio monolito que recuerda a las víctimas del terrorismo en bilbao ante esto lo que ustedes deben hacer es exigir a eta que condene todos estos hechos pero a ustedes apenas les oímos nada

que matar estuvo mal usted ha dicho hoy por la mañana que es nuestro empeño y que no vamos a permanecer callados pero esto no basta

a eta y comparta con los demócratas una estrategia para deslegitimar y derrotar a eta esto es lo que básicamente tiene que hacer asesores a sueldo nos cuentan que todo va muy bien nosotros le décimos que si que bien es cierto que eta ha sido derrotada policialmente prácticamente está derrotada

la manipulación de la historia y el olvido de las víctimas y hay

en ese sentido muchísimas cosas y el gobierno no ha estado a la altura durante todos estos años todo lo contrario ha fomentado

equidistante entre los victimarios y las víctimas autogobierno usted lleva tres años dando la murga en relación al autogobierno y al nuevo estatus pero sin concretar nada y sin presentar una propuesta concreta

eso sí derechos que no existen exige no sé qué al gobierno de españa e incluso le insta a respetar determinados derechos que no existen pero olvida que usted es representante ordinario del estado en euskadi

y hacer que se cumpla y me da la sensación que visto lo visto que usted no tiene esa intención sino todo lo contrario

observemos algunos de los acontecimientos de los últimos días hace diez días compareció el portavoz de su gobierno en una rueda de prensa cuyo contenido podemos resumir una sarta de manipulaciones y falsedades acerca del autogobierno

del partido nacionalista vasco y para esquivar sus propias responsabilidades de gobierno en las áreas de las que dispone de competencia una rueda de prensa que explica bien cómo se las gasta este gobierno una rueda de prensa y una trayectoria política para esgrimir

de toda la vida la culpa de todo siempre la tienen otros y el partido nacionalista vasco nunca es responsable de nada

defendiendo ustedes durante todos estos años como si no tuviera un amplio abanico de competencias que pudiera ejercer como si no hubiera problemas aquí en euskadi que usted mismo y su gobierno

en fin como digo manipulaciones y falsedades acerca del autogobierno y es que decir que cumplir el estatuto en su versión nacionalista casi duplicaría

es intentar engañar a la sociedad vasca decir que nos conviene el traspaso del sistema de la seguridad social ocultando el agujero de casi dos mil millónes de euros que sufriríamos es intentar estafar a la sociedad

es sencillamente una patraña yo les pido que no jueguen con el presente y el futuro de miles de personas en euskadi porque es algo muy serio

con un modelo propio para euskadi debido a que el mercado laboral vasco presenta salarios más elevados

es otra media verdad y por lo tanto es una mentira decir que el autogobierno está en riesgo de caer en la irrelevancia y que la alternativa es la bilateralidad con el estado

político sobre todo cuando el gobierno vasco sigue sin presentar una propuesta concreta que pudiera debatirse en esta cámara lo cual por cierto añade

una propuesta concreta son incapaces de decir exactamente qué es lo que quieren y cómo van a llevarlo a cabo por cierto hablan de irrelevancia

a los ciudadanos vascos a mí lo que me parece irrelevante

la actividad legislativa la actividad política todo lo que se refiere a medidas a propuestas para modernizar euskadi eso sí que es irrelevante eso sí que es una irrelevancia absoluta pero no acuse a otros de lo que usted no hace no acuse a otros gobiernos de lo que usted

competencias suficientes como para resolver muchos de los problemas que padecen los ciudadanos vascos usted representante ordinario del estado en nuestra comunidad

y esto que voy a decir me parece muy grave está esperando a ver qué es lo que ocurre en cataluña está usted esperando a ver qué es lo que ocurre en las próximas elecciones

y dar nuevos pasos hacia la independencia y eso me parece una deslealtad absoluta ya digo que usted es el representante ordinario del estado en nuestra comunidad autónoma sin embargo se mantiene agazapado a la espera de que las cosas vayan a peor en el conjunto de españa para que el partido nacionalista vasco pueda sacar ventaja política y nuevos privilegios y eso

tratar de que las cosas vayan mal en el resto de españa para llegado el momento

que vulnere que vaya más allá de la constitución española decir que es necesaria una relación bilateral y pactada con el gobierno del estado es querer seguir viviendo del cuento nacionalista una nueva etapa hasta alcanzar el objetivo final la independencia de euskadi

nos lo recuerda en esta cámara cuando nos dice que ustedes siguen siendo nacionalistas

el momento presentar su propia propuesta de independencia decir venir a decir o en fin dejar caer que todos nuestros males vienen de españa es dimitir de las responsabilidades que le son propias además de ser una falsedad monumental ya digo que es dimitir

y tratar de desviar la atención sobre sus competencias no reclamen tanto

y gestionen mejor las competencias de las que ya disponen de las que ya dispone el gobierno vasco en materia de educación de sanidad de infraestructuras de ertzaintza y de tantas otras cuestiones ejerzan bien sus competencias cosa que no han hecho hasta ahora

al gobierno de españa de no transferir determinadas competencias esta es la actitud habitual del partido nacionalista vasco todo es culpa de otros y el partido nacionalista vasco no es responsable de nada este es el resumen de la trayectoria política de su gobierno y del partido nacionalista vasco da igual que ustedes hayan gobernado euskadi casi siempre da igual que ustedes gobiernen las tres diputaciones da igual que ustedes gobiernen en innumerable municipios de lo malo que nos ocurre

y usted no asume sus propias competencias y competencias ciertamente tiene muchas por lo tanto dejen de hacer victimismo y gobiernen

asko daude egiteke ejemplos de inacción política tres años después

una propuesta concreta para reformar el entramado institucional vasco tres años después seguimos sin la necesaria modernización del sector público societario tres años después seguimos sin una ley de transparencia

de administraciones públicas tres años después seguimos sin una ley de empleo público

de empleo tres años después ustedes siguen en fin

todo aquello que se comprometieron y muchas cosas más que no se comprometieron pero que son indispensables llevar a cabo hablaba usted hoy por la mañana

degradación es la de su gobierno eso sí que es degradación e irrelevancia y falta de actividad política falta de capacidad para resolver

deje de echar balones fuera y de atacar al resto y mire lo que usted y su gobierno han hecho durante estos tres años mire las cosas que hay que hacer en euskadi que todavía siguen pendientes observe la realidad social de la sociedad vasca observe sus problemas observe euskadi y tantas cosas que deben hacerse en euskadi

internamente en fin déjense de fábulas y leyendas respecto a la supuesta existencia de un enemigo externo y ejerzan correctamente las competencias que ya tienen resuelvan problemas resuelvan problemas ocúpense

y dejen de tratar de vendernos como modélica su gestión en euskadi por cierto que es lo que ha hecho hoy por la mañana sí analizamos la evolución de determinadas variables y comparamos a euskadi con el resto de españa queda claro que comparativamente euskadi no está mejor

y ahí podemos recurrir a datos como tasas de paro ocupación o tasa de actividad y esto es responsabilidad suya esto es responsabilidad de su gobierno hoy defiende la bilateralidad y el derecho a decidir incluso

un término tan ridículo como nación foral pero siguen negándose a presentar una propuesta concreta de reforma de nuestro marco de convivencia a que esperan

la nuestra que consistiría básicamente en impulsar todas las reformas que euskadi y españa necesita desde la reforma de la constitución española pasando por la reforma del

o la reforma de la ley de territorios históricos y tantas otras cuestiones que

propuestas pero desde luego también tenemos claro teniendo en cuenta la situación del país a día de hoy y el embate de los nacionalismos que a día de hoy

defender la constitución española y el estado de derecho esa es nuestra primera obligación en el congreso de los diputados y también aquí en el parlamento vasco

que lo que pretenden es levantar muros entre conciudadanos nosotros ante esa situación lo que vamos a decir es que vamos a seguir defendiendo la constitución española

catalanes o vascos no se salgan con la suya tenemos propuestas pero nuestra obligación hoy es defender como decía fernando savater defender argumentalmente sin remilgos ni circunloquios a españa

sino como estado de derecho que sirve de anclaje institucional a nuestra ciudadanía en cataluña por cierto no estamos viviendo un pulso entre el gobierno

y los nacionalistas sino un jaque a los derechos y libertades de cada uno de nosotros los ciudadanos realmente existentes lo que pase allí

porque aquí también puede pasar cosa parecida en los próximos meses

de bajar la guardia sino todo lo contrario y como decía antes usted se mantiene al acecho a la espera de acontecimientos presto a aprovecharse de la debilidad del estado nosotros en fin vamos a defender todas las reformas que sean necesarias pero

lo que hay que defender es el estado de derecho y decir tantas veces como sea necesario que es mejor unir que separar que es mejor derribar fronteras que levantarlas y que es absurdo y que es profundamente reaccionario levantar fronteras entre conciudadanos que pretenden vivir juntos vamos a defenderlo en todos los lugares también en euskadi para cataluña

ese es nuestro objetivo defender más igualdad y más bienestar para todos y repetiremos tantas veces como sea necesario que el derecho a decidir que ustedes plantean falacia que el derecho a decidir se trata de algo consustancial a la democracia misma y lo tenemos todos lo que en cambio nadie tiene es el derecho a decidir que los demás

o cual asunto de interés público sea la independencia de cataluña la reforma de la constitución española o el modelo territorial del estado cuestiones que nos afectan a todos por lo tanto el derecho a decidir que ustedes enarbolan es una patraña aunque conviene añadir que el derecho a decidir sí existe pero que corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles y que para reformar la constitución española deberemos hablar

y que para reformar o cambiar el modelo territorial del estado deberemos hablar todos los ciudadanos españoles le digo esto señor lehendakari no porque me vaya del tema sino porque

conviene recordar aquí cuáles son los límites legales establecidos en la constitución española cuáles son los límites que tiene usted y que tenemos todos para cambiar la realidad en la que vivimos

vasco incapaces inactivos e insensibles un lehendakari y un gobierno vasco que recurren al victimismo para esconder su incapacidad

y su insensibilidad un lehendakari y un gobierno que con sus actuaciones concretas fomentan la teoría del conflicto político e indigna

del terrorismo un lehendakari y un gobierno vasco que no impulsan de reformas que euskadi necesita un lehendakari y un gobierno vasco que no resuelven los problemas

y un lehendakari y un gobierno vasco que no concretan en nuevo estatus que pretenden

a la espera de lo que ocurra en otros lugares y esto es cobardía política por lo tanto señor lehendakari un gobierno vasco inerte incapaz

perfectamente prescindible e irrelevante este es el resumen que hacemos nosotros de sus tres años de legislatura eskerrik asko maneiro jauna

lehendakari entramos en la recta final de esta legislatura y en este pleno de política general toca hacer balance

de estos tres años de su gobiernos vasco y para ello creo que lo más honesto y para poder hacer

llegaron al gobierno usted calificó entonces la situación económica de emergencia nacional y se comprometió con todos los vascos a afrontar las crisis y abro comillas de verdad tomando medidas de verdad

de verdad incluso hablo de un auténtico reinicio de euskadi

cree el lehendakari de verdad después del balance que ha hecho esta mañana que estamos en el auténtico reinicio de euskadi

el paro es el principal problema de los ciudadanos la verdad es que en euskadi estamos reduciendo algo el paro pero muy poco

del dieciséis coma seis por ciento de la población y en estos momentos

medio punto en tres años medio punto en tres años si vamos a otro dato el producto interior bruto

datos del último trimestre a un ritmo del dos coma siete por ciento

por qué le pongo estos dos datos encima de la mesa lehendakari porque ahora que se inicia un ciclo de expansión en la economía todos pensábamos

que el crecimiento en euskadi se iba a hacer con otro ritmo con otro aire el hecho de que euskadi

no entraba en sus previsiones entre otras cosas porque nunca ha sido así perola realidad es que hoy tres años después del inicio de su mandato

que estaban mucho peor que nosotros pero no se trata de le ponga en comparación con otros lugares de españa porque seguramente si yo le saco unos datos usted podría sacar otros yo creo que realmente es más honesto es haciendo un análisis de cuáles son nuestros instrumentos de cuáles son nuestras herramientas y capacidades hacer un análisis de cómo estamos en estos momentos en euskadi en comparación con el año doce

coge la responsabilidad del gobierno vasco porque su gobierno los vascos contamos con un abanico de competencias extraordinario que permitiría a su gobierno ser más ágil más innovador más eficaz pero claro para eso es necesario modernizar e innovar y sobre todo hay que querer

no ha querido cómo se puede medir la capacidad de gestión de su gobierno que es lo que a mí me gustaría hacer

pues en primer lugar atendiendo a la actividad legislativa y este primer dato lehendakari ya les pone en evidencia cinco leyes aprobadas en este parlamento cinco leyes remitidas por este gobierno

lehendakari puede asegurar en esta cámara que su gobierno ha afrontado de verdad

aprobadas en estos tres años cinco leyes que ahora mismo están teniendo efecto en la sociedad vasca no las que

en una situación como usted mismo decía que era de emergencia nacional y que requería de todos nuestros esfuerzos

tomar medidas de verdad como usted decía bost lege hiru urtetan

harrigarria da zuen kudeaketa gaitasuna esa sería la primera forma de medir cuál ha sido su actividad y la verdad como le decía les deja en evidencia dos presupuestos una ley sobre los suelos contaminados una para garantizar la paga extra de los funcionarios

estadístico sigamos otra de las variables para medir su capacidad de gestión es la de analizar qué están haciendo

el dinero previsto porque eso quiere decir a qué ritmo están ustedes trabajando

y lo primero que llama la atención lehendakari son las partidas que están a cero que a treinta y uno de agosto están a cero

que ver con la actividad económica con esa que genera empleo

nuestra prioridad esas partidas que están a cero son las siguientes fomento del emprendimiento presupuestados

plan renove de máquina herramienta presupuestados dos millónes gastados cero comercio urbano presupuestados dos millónes gastados cero modernización de comercio presupuestados tres millónes setecientos cincuenta mil gastados cero

que llama la atención lehendakari y que me parece que es más importante todavía es el de la inversión la ejecución en la inversión

es la capacidad que tiene este gobierno de incidir en la actividad económica para generar empleo es ese valor añadido de este gobierno que con su gestión logra incentivar la creación de empleo pues bueno llama la atención que si uno hace una valoración de todos los departamentos

se da cuenta que están todos por debajo del cincuenta por ciento y esto es muy llamativo lehendakari es muy llamativo por ejemplo vivienda

diecisiete millónes inversión en hospitales es que le he escuchado esta mañana todas las inversiones que decía que se habían hecho y la verdad es que de los treinta y siete

en educación veintisiete millónes presupuestados ejecutados quince millónes esto contrasta por otro lado con otras partidas que a treinta y uno de diciembre ya están ejecutadas por ejemplo el bec los catorce coma cinco millónes que nos cuesta a todos los vascos presupuestado y pagado igual que la renta de garantía de ingresos que de los cuatrocientos sesenta y uno millónes presupuestados ya nos dicen que se los gastan y que otra vez más se han quedado cortos

y hemos llegado ya al setenta por ciento del techo de deuda que tenemos permitida como administración pero vuelvo al tema de las inversiones

y van a una ejecución presupuestaria muy baja en un momento como este

y también por cierto espera como agua de mayo una bajada de impuestos vemos estos indicadores tan flojos de inversión y da la sensación lehendakari de que este gobierno va con el freno de mano en el gasto

puede tener algo que ver estos datos que estamos conociendo en esta última semana unos datos preocupantes que parece que la recaudación no va al ritmo

que no va al ritmo sobre la previsión que su gobierno hizo de crecer un seis coma diecisiete por ciento quizás es que

cuáles van a ser los ingresos para luego poder establecer con rigor el gasto

las consecuencias por no haber sido cautos y responsables en sus previsiones por eso nos han anunciado más recortes

ordaindu beharko dugu hiritar guztiok zuen kudeaketa kaxkarra el pinchazo en la recaudación lehendakari que acabamos de conocer

demasiado inquietante los datos objetivos de recaudación hasta el pasado mes de agosto son un bofetón de realismo que dice muy poco de su planificación

o de la manera por la que llevan esta sociedad y que nos puede salir muy caro a los vascos a mi juicio la floja recaudación de cumplirse estaría evidenciando una serie de problemas estructurales en el país vasco ciertamente preocupantes después de una subida de impuestos que no es novedosa como hacía ver usted esta mañana

con una economía en expansión y la recaudación bajando en el país vasco hay algo que no cuadra lehendakari que inquieta que exige de su gobierno una aclaración y que por cierto esta mañana ni siquiera usted lo ha mencionado sus previsiones eran erróneas

una duda más quizás así podamos entender esa forma que tienen de ejecutar el presupuesto intentando no gastarse más

puedan cuadrar las cuentas a nosotros nos parece un error lehendakari un error que el ajuste en este presupuesto se haga a costa de las inversiones y no

estar trabajando en tratar de hacer más eficiente esta administración y reducir los gastos por cierto

los planes de reactivación económica a los que se ha referido usted esta mañana firmados con el partido socialista esos que como le decía a los que se ha referido esta mañana cuando se iba al capítulo de cómo se iban a financiar todas las acciones de esos planes hacían referencia a que

iba a recaudar con la lucha contra el fraude es más pone en esos planes lehendakari vea la parte de la financiación

lo que iba a salir lo que iba a aflorar de la lucha contra el fraude a razón de dos mil millónes por año y usted no nos ha dicho nada de eso

vienen a mi memoria unas palabras del exdiputado general de bizkaia que decía que pueden estar tranquilos

los estafadores porque él nunca publicará sus memorias hoy

de cuentas eso no sé si entra también dentro de sus compromisos en aquel debate del dos mil doce un nuevo gobierno y una nueva forma de gobernar dijo entonces gobernar lehendakari significa asumir el liderazgo y enfrentarse a dificultades a negociaciones que no son fáciles como la del diálogo social lehendakari usted nos hablaba esta mañana que su prioridad es la creación de empleo

somos concientes de cuál es la situación pero para cuándo un acuerdo en euskadi no ya fuera es que dentro de la propia administración le recuerdo como está la situación

de dificultad sabemos que hay un sindicato que no atiende a razones lo sabemos

sentarles y acordar y si no se sientan habrá que avanzar pero lo que no se puede es aceptar su bloqueo y luego eso sí echan en cara cuando otros proponen otras fórmulas como lo hizo en su día adegi

esa también lehendakari es una responsabilidad de gobierno o creen que a otros gobiernos

pero nosotros creemos que hay que impulsar nuevos modelos de relaciones laborales que los trabajadores participen en las empresas creo que eso es algo favorable que ustedes podían haber liderado haber promovido pero que no la han hecho y que esta mañana nos dicen que efectivamente nos remitirán a esta cámara un proyecto de ley sobre economía social

por cierto esta mañana no ha dedicado ni una sola palabra

que es el referente de la economía vasca no nos ha dicho nada como le decía hay que buscar un nuevo modelo de relaciones en el seno de las empresas basadas en el entendimiento y no en la confrontación porque nuestra prioridad debe ser

que podrían trabajar y no pueden en estos momentos y en esa prioridad

con toda su capacidad desplegada lanbide usted lo ha dicho esta mañana efectivamente ha habido problemas es que fíjese cinco años dedicados

que fue en enero de dos mil diez cuando esta competencia llegó a euskadi y en el año dos mil quince cinco años después ahora mismo en septiembre

un ente como lanbide que tiene que estar destinado a buscar las posibilidades de los trabajadores hacia fuera está cinco años mirándose hacia dentro y debatiendo hacia dentro cómo organizarse para dar esos servicios

cabe preguntarse es si estos años que han estado

no han tenido mucho que ver con ese lento caminar en la creación de empleo de euskadi yo creo que sí

las dos competencias que tiene lanbide esos dos ámbitos que son sobre todo

y los perceptores de la renta de garantía de ingresos eso también quizás tenga mucho que ver con la tasa de intermediación de lanbide que está en el dos coma cuatro por ciento

como usted dijo y que sigue siendo necesario actuar porque no lo ha hecho tenemos la obligación de modernizar euskadi yo coincido con usted

pero desafíos sobre los cuales no se puede actuar con recetas del pasado y no podemos permitirnos el lujo de esperar a ver qué pasa

es alto muy alto y lo pagan sectores concretos y si no mire los datos de los jóvenes los jóvenes que van esta mañana yo le escuchaba decir que teníamos que ser capaces de atraer talento

nos concentramos en que los nuestros no se vayan porque con el talento que efectivamente existe en euskadi vamos a ver si generamos las posibilidades para que se queden aquí

que cambiar de actitud hay que pasar de la confrontación a la colaboración porque como ustedes siempre están en esa confrontación siempre buscando esa confrontación

de por el camino perder fondos europeos para la implantación de la formación profesional básica pero además lehendakari

sobre la necesidad de impulsar la investigación yo le pregunto qué ha ocurrido con las cien becas de colaboración para la investigación suprimidas para jóvenes vascos universitarios

enumerar los programas del gobierno en inglés y yo decía muy bien

si es que usted está poniendo el listón a un nivel que todavía no es capaz de implantar en las aulas por supuesto que el inglés es necesario

que cuando habla de esos consensos especificara que los consensos son entre nacionalistas y que no son transversales y no son plurales y no tienen en cuenta la diversidad que existe

es que los jóvenes el cuarenta y cinco por ciento de los jóvenes vascos está en paro y solo dos de cada diez están emancipados

y más colaboración colaboración y apoyo como las que también necesitan las familias vascas lehendakari esta mañana le he escuchado decir que sí que sí que es importante lo de las familias no pero claro

las ayudas por hijo por qué recorta las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral y por qué no impulsa una bajada de impuestos que eso también le vendrá muy bien a todas las familias vascas porque siguen disminuyendo los nacimientos casi la mitad de esas madres tenían

de decadencia son problemas estructurales

por eso cuando ustedes hablan ahora que una seguridad social

garantizaría las pensiones yo le quiero decir lehendakari si usted es capaz de subirse a esta tribuna y decir que efectivamente un sistema vasco de seguridad social

sus pensiones en las mismas condiciones porque mientras usted es lehendakari sigue descendiendo

y cada vez hay más pensionistas como decía el señor toña en pocos años un tercio de la población vasca será

esto de la reclamación de la competencia es muy legítimo y me parece muy bien pero teníamos que ser conscientes también de cuáles son las consecuencias de esas competencias

hoy no valen hay que gestionar con menos y hay que ser creativos y ese era su reto lehendakari

como balance creo que estos tres años de gobierno no han impulsado de verdad medidas asumiendo los problemas

nacional para modernizar euskadi necesitamos un gobierno vasco que innove más ágil y más competitivo pasando ese segundo eje de la legislatura de paz y convivencia usted al principio de la legislatura dijo que tenemos mucho que compartir sabiendo que necesitamos un acuerdo entre diferentes

que matar estuvo está y estará siempre mal usted esta mañana ha dicho que la sociedad vasca es una sociedad con ética y yo lo comparto pues entonces habrá que empujar a aquellos que todavía no aceptan

como no lo consigue ahora dice usted que tenemos que hacer algo todos que tenemos que movernos y hacer autocrítica por qué existe algún camino posible para configurar una sociedad como la nuestra sobre unos valores democráticos y de convivencia si se piden esfuerzos por igual a quienes siempre han condenado la violencia y a los que hoy todavía no lo hacen

o blanqueamos el pasado o nos miramos honestamente en el espejo de la historia para deslegitimar el terrorismo y escuchando sus declaraciones en esta semana después

cree que lo mejor era que no detuvieran a esos etarras en eso que ustedes llaman fin ordenado de eta qué papel juega la justicia eso que ustedes llaman fin ordenado de eta significa que ustedes jueguen a mediadores de los intereses de eta y que por tanto

no es una derrota sino una integración en la sociedad vasca esa es su manera de deslegitimar el terrorismo yo creo que no hay justificación posible para la violencia y nadie excepto un solo grupo aquí justifica la violencia porque el resto no justificamos ni la de eta ni la de los gal

ni ninguna de todas ellas pero es una aberración creer que quienes hoy están encarcelados por asesinato o a quienes se pretende homenajear habiendo sido miembros de eta han sido personas que han dado lo mejor de sí mismas y ese es el nudo de la cuestión

de la misma manera que no se puede mezclar al maltratado con el quemador de cajeros al acosador escolar al etarra que mata al ciudadano que se enfrenta al agresor o el yihadista que muere matando todo ello es violencia sí

usted reconoció en el mes de junio que llegamos tarde a la sensibilidad y respuesta que merecían las víctimas cómo es posible que apenas tres meses después de esa declaración caigan en el mismo defecto de falta de sensibilidad y nos diga que la sociedad vasca en estos momentos

sabe cuál es el problema que ustedes todavía no han decidido entre si blanquean el pasado o de verdad nos centramos en mirar honestamente la historia y deslegitimar el terrorismo

y solo la comparten con quienes todavía hoy no reconocen el daño causado por eso le propongo lehendakari que empecemos como dejamos la legislatura anterior

nos reunamos en una nueva ponencia que sí que tenga sobre la base y que tenga como

la deslegitimación del terrorismo se lo digo así de claro lehendakari porque es preciso recordar que los asesinatos de eta supusieron el noventa y dos por ciento de total de víctimas mortales del terrorismo y que los vascos

sin lastres del pasado y finalmente lehendakari paso al capítulo que usted denomina

en el fondo de este debate ustedes han visto una vez más que esto les brinda la posibilidad de prolongar su agenda de reivindicaciones y por tanto sus carreras políticas porque tenemos todo

de la bilateralidad y realmente

ahora también nos incluyen otro concepto nuevo que es el de la nación foral un tanto nostálgico eso es un concepto del siglo diecinueve de los románticos vizcaínos lehendakari

ese es el gran concepto que aporta el nacionalismo en el siglo veintiuno

ustedes dicen que necesitamos un nuevo encaje pero si ya está hecho el encaje lehendakari

sí sí tenemos reconocida nuestra singularidad nuestro autogobierno y nuestra capacidad fiscal única en europa

a ustedes precisamente les molesta esa euskadi plural y por eso nos aparecen ahora con esto de la nación

qué es esto lehendakari es que suena muy viejo y muy rancio perdóneme es que estamos en el siglo veintiuno en la globalización en la cooperación

y ustedes nos quieren aquí encerrar en un nuevo concepto bueno nuevo del siglo diecinueve el caso es que

es saber si las estamos gestionando bien qué balance hace su gobierno de la gestión de las transferencias actuales el otro día les oía decir que el estatuto está en crisis

lo que está en crisis es su capacidad de gobierno y estos tiempos son una prueba de ello parece que aquí los buenos gestores

presumían solo lo eran en tiempos de bonanza y ay amigo cuando hay crisis

de balance de sugestión porque qué elemento o hecho diferencial han marcado ustedes en la gestión de esta crisis económica tenemos teniendo todo nuestro autogobierno porque no será

para hacerlo a nuestra manera por eso lehendakari en esa ponencia de autogobierno el partido popular quiere proponer analizar la cuestión la gestión del autogobierno

algo muy distinto de lo que efectivamente sí sí porque esos son los que están reconocidos en la constitución y no ese nuevo concepto que proponen los socialistas

nosotros claro que creemos en la foralidad esa que está reconocida en la constitución todo lo demás todas esas propuestas que están encima de la mesa por parte

precisamente lo que van es en contra del mantenimiento de esa foralidad

eliminar los privilegios derivados de la redacción de mil novecientos setenta y nueve tal como por ejemplo

al concepto de los aforamientos de los cargos públicos promover la transparencia y los mecanismos para dotar de independencia a los órganos de control de poder

las potencialidades del actual estatuto no están explotadas y menos aún la capacidad de gestionar el concierto económico a nuestro juicio lo que necesita el país vasco

y voy concluyendo en un mundo en el que constantemente suceden cosas y todo cambia rápidamente es imposible que las tensiones no aparezcan lehendakari

es asumir la realidad europea la de la necesaria colaboración intergubernamental

a interesada a cuenta de esa recentralización del supuesto agravio que siempre viene desde madrid

pasa por que euskadi recupere el protagonismo en españa y en europa ese es el ámbito en el que mejor rinde el talento

que es de lo que se trata y de lo que usted a lo que usted se comprometió hace tres años le recuerdo lehendakari que es usted un lehendakari

del partido socialista aparte del poder ustedes sabrán cuál es el beneficio porque por los resultados de estos años el resultado deja mucho que desear finalizo diciendo que

analice sinceramente el avance de su gobierno en estos tres ejes que usted fijó para esta legislatura y dígame realmente hemos avanzado al ritmo que usted pensaba

en materia económica y social es esta toda la capacidad de gestión de su gobierno mire su atonía su lenguaje

se han convertido en su marca pero en lo sustancial en lo real

de describirle hay mucha inacción parsimonia demasiadas prioridades nacionalistas que no ciudadanas euskal herritarrek gehiago espero genuen zugandik

y sin lugar a dudas los vascos nos esperamos mucho más muchas gracias eskerrik asko

arratsalde on arratsalde on lehendakari sailburuok legebiltzarkideok lehendakari le queda un año de legislatura perdió el primero no pierda el último no se deje arrastrar por los acontecimientos

usted y su partido solo tenían un plan llegar a ajuria enea pero no tenían un plan para los vascos no tenían un plan sobre cómo construir el futuro de este país

con gestionar el presente y ha renunciado a liderar el país llegó con un plan de recortes de derechos y servicios públicos y desperdicio un año

y rectificó hoy presume precisamente de todas las políticas que le obligamos a rectificar pero rectificó obligado por su precariedad parlamentaria

ajuria enea pero no porque pensara que con sus políticas los que perdían de verdad eran los ciudadanos vascos y entonces entonces atendió a lo que decíamos los socialistas

y a los suyos porque los socialistas anteponemos siempre nuestro compromiso con los ciudadanos vascos nosotros estamos en política para sumar esfuerzos nunca para derribar gobiernos eso y solo eso es lo que le permite a usted abordar este último año de su mandato

ponga a trabajar a su gobierno se lo digo porque usted sigue refugiándose en datos económicos que no dependen de su gestión que dependen o del banco central o del precio del petróleo o de decisiones de la comisión europea

con esos datos sobrevuela lo esencial los daños estructurales que la crisis ha dejado en los cimientos de este país el aumento insoportable de las desigualdades y el empobrecimiento de los trabajadores y las clases medias y son muchos los ciudadanos que piensan que sus hijos no tendrán las mismas oportunidades que ellos tuvieron

por eso desde ahora le anuncio que no llegaremos a ningún acuerdo que suponga ni un solo recorte

ni en derechos de los ciudadanos perdió el primer año pero los dos siguientes los hemos aprovechado mucho mejor y digo hemos porque los socialistas le hemos aportado y alternativas para hacerlo ahora le pedimos que se atreva a asentar unas bases sólidas de salida de esta situación euskadi es más rica sí pero los vascos

como tantos europeos aquí también miles de trabajadores madrugan cada mañana para ganarse su pobreza en un trabajo precario después acuden a lanbide

ha aumentado así lehendakari tal vez se salga de la recesión económica pero no saldremos de la crisis social

y empiezo por el empleo porque esa es la primera de las preocupaciones de los ciudadanos los socialistas no estamos aquí para amargarle la vida como a veces algunos quieren interpretar

hay más contrataciones y menos personas apuntadas en lanbide es así porque hay más recursos orientados al empleo a los servicios públicos

social los socialistas hemos facilitado esos recursos hemos puesto sobre la mesa medidas que dan oportunidades a los parados de larga duración y a quienes aspiran a empezar

pero su gobierno se ha quedado corto lehendakari los gestiona pero ha sido incapaz de establecer una estrategia global para que esos empleos sean decentes y ahí los datos

son a tiempo parcial hay menos parados pero la precariedad es la llave de acceso al mercado laboral más de la mitad de los desempleados llevan más de dos años sin trabajo

son trabajadores con menos de seiscientos dieciséis euros al mes y la mitad de ellos llevan así

le hemos pedido un plan para impedir los delitos continuos contra los trabajadores y lo estamos esperando aún debe ser un plan para que los inspectores vigilen de forma exhaustiva esos nuevos contratos esos falsos autónomos esas horas extras no cotizadas y pagadas de forma irregular no pongas solo inspectores a vigilar a los empleados que subsisten como pueden ponga a vigilar sobre todo

tenemos competencias de salud laboral y en dos mil catorce a aumentado la siniestralidad no conocemos un plan para atajar este repunte de accidentes y estos accidentes tienen mucho que ver con esa precariedad tenemos competencias en formación continua los programas de formación se encuentran paralizados

a qué espera para poner en marcha los planes que necesitan miles de trabajadores competencias en diálogo social tardó en convocar la mesa en la segunda foto ya tenía unos acuerdos básicos y no ha cumplido ni uno el gobierno lehendakari va a esa mesa a liderar no a tomar notas así que

ponga en marcha ya el programa de edificación sostenible recupere trabajadores de la construcción favorezca la rehabilitación en las comunidades de vecinos ponga en marcha ya el reconocimiento de las competencias profesionales

impulse ya el contrato de relevo para los jóvenes les urge a los jóvenes su único proyecto para ellos no puede ser que aguanten que no busquen su vida fuera de euskadi como dijo en consejero hace unos meses necesitan alternativas por un lanbide eficaz porque lanbide hoy es un portaviones varado tenemos líneas de actuación presupuestos cobertura política empresarial y sindical

y mirar al futuro es conectar todos los recursos coordinarlos

los socialistas sí estamos mirando más allá los socialistas le hemos recordado que muchos de esos instrumentos se lo hemos propuesto nosotros y hoy le quiero ofrecer una idea más un plan concreto para no perder este año

sumando todos los recursos que tienen las distintas áreas de su gobierno con los recursos de las demás administraciones vascas un plan para recuperas los trabadores que llevan años buscando empleo y con pocas esperanzas

ofrézcales una formación completa para que aprendan nuevas técnicas de eficiencia energética y sostenibilidad aplicadas a la construcción y a la edificación ya dispone de recursos para ello nosotros los introdujimos en los últimos presupuestos las empresas de rehabilitación

la renovación el ahorro energético y la accesibilidad los ayuntamientos también podrán contar con ellos en sus planes locales en sus proyectos de regeneración

le propongo que gane este año para esos trabajadores que no ven un futuro siente en una misma mesa a todas las instituciones conecte todas las necesidades

tenemos uno de los parques de viviendas más viejos de europa tenemos miles de familias con dificultades económicas para poder afrontar esas reformas necesarias tenemos problemas en accesibilidad

miles de trabajadores sin empleo que saben de construcción y que necesitan formación tenemos un compromiso de reducir el consumo energético tenemos líneas de ayudas dispersas

todas esas herramientas con este plan de paso avanzaremos en el empleo verde uno de los nuevos nichos de empleo apueste de forma decidida por él y también por el

o el empleo socio sanitario y en esto le recuerdo otro compromiso pendiente la creación de un fondo de cohesión social junto con las diputaciones sentemos las bases para el modelo de la protección del futuro con investigación con infraestructuras y programas piloto superemos en debate de las ayudas y hablemos ya de de cómo articular de verdad

porque sí hay que hacer una reflexión sobre el modelo de protección que queremos en esta legislatura hay quien ha querido enfrentar a colectivos que necesitan ayuda y yo no voy insistir en esa lamentable polémica pero sí quiero decir que me siento orgullosa

porque hemos visto que la solidaridad ha estado por encima de los intereses electorales

porque hemos sabido construir una sociedad que no quiere dejar a nadie tirado y lo estamos viendo estos días también con la rápida respuesta social e institucional que hemos dado ante la emergencia

y me siento orgullosa como responsable política porque este parlamento ha sabido estar a la altura del espíritu solidario de los ciudadanos a los que representamos la gran mayoría de los parlamentarios de esta cámara creemos que el fraude social

rotundamente sí como todos los fraudes pero este

que cada vez la necesitan más trabajadores de sueldos ínfimos que aunque la economía mejore estas ayudas van a seguir siendo necesarias durante muchos años y aquí quiero añadir lehendakari otra alerta social en euskadi hay casi

monoparentales por viudedad divorcio

en solitario de la maternidad o la paternidad la inmensa mayoría

por tanto la pobreza tiene cada vez más nombre de mujer de nuevo ellas son las paganas de la crisis pero muchas no nos piden ayuda económica nos piden apoyo institucionalidad como el de las familias numerosas necesitan otras políticas de natalidad

de vivienda o de educación como las hay para las familias tradicionales ha costado mucho conquistar el derecho de las mujeres para tomar sus propias decisiones y no puede ser que decidir ser madre se convierta en un nuevo techo de cristal

sigue siendo atacada este verano hemos levantado nuestras voces ante las agresiones sexuales que esas voces perdidas en otros asuntos tienen que estar en nuestra agenda y yo le pido hoy de nuevo que vuelva a pensarse la creación de una ventanilla única para las mujeres agredidas porque las víctimas no tienen por qué conocer el organigrama del gobierno

que ir queremos un único órgano que supervise y coordine todos los recursos para prevenir sensibilizar y atender los casos de violencia de género

lehendakari esta es la fotografía social de hoy en noviembre le dedicamos una sesión parlamentaria y la mayoría de las resoluciones no se han cumplido ahí tiene usted las bases con las que construir una iniciativa para el futuro de este país y no pierda el año que nos queda para atender urgencias que le esperan porque cuándo va a responder a los que no pueden pagar las facturas de luz y gas nosotros le hemos ofrecido presupuesto

hay organizaciones sociales dispuestas a colaborar cuándo lo va a hacer y qué pasa con los planes de refuerzo alimentario en los centros educativos que aprobó esta cámara tampoco sabemos qué servicios públicos quiere para los próximos años sabemos cómo los hemos garantizados estos últimos tres años

y porque con la reforma fiscal le hemos facilitado los recursos para mantenerlos pero los servicios públicos necesitan de trabajadores que los hagan posibles y su ejecutivo vive en conflicto permanente con ellos con quienes hacen posible

ha convocado ofertas de empleo claramente insuficientes en sanidad y en educación en e i te be con la ayuda de eh bildu y aplicando la reforma laboral de rajoy ha consumado el primer ere de una empresa pública mientras los vascos siguen huyendo de su radio televisión pública la ertzaintza no tiene un modelo definido para los próximos años su horizonte se acaba en el dos mil dieciséis este es el presente de esos servicios cuál es el futuro

ha renunciado a negociar con madrid mejoras en la tasa de reposición como sí hizo el ejecutivo que le precedió ha renunciado a un plan que garantice el relevo generacional como le venimos planteando está pendiente la ley de empleo público y al nuevo borrador le sigue faltando el acuerdo sindical y el ces ya le ha dicho que la mire y la corrija antes de traerla a esta cámara por cierto

el análisis que hace sobre su apuesta por la innovación y la investigación le debería hacer replantearse el afán de su gobierno por los power points

la mantiene por debajo del listón que heredó del lehendakari patxi lópez pero además

es poco eficaz pocas patentes publicaciones científicas sin resultado práctico doctores en paro por falta de conexión entre formación y tejido productivo

lehendakari hace falta conectar la investigación con la industria sobre todo con las pymes conectar al conocimiento con el desarrollo del país necesitamos un compromiso a largo plazo y los socialistas

se llama pacto por la investigación necesitamos establecer un equilibrio entre la investigación básica la aplicada el desarrollo tecnológico y la innovación

en este parlamento eso es apostar por la competitividad eso es levantar la vista mire también al futuro con nuestra educación hay que impulsar con convicción el trilingüismo ahora lo hace a trompicones y de forma desigual según los centros y fíjese

porque hay alumnos que pueden reforzar el inglés fuera de las aulas esos van a poder ser competitivos en el futuro pero otros los de menos recursos no pueden se conforman con lo que hay

se juega ya en nuestras aulas y en la educación trilingüe sea decidido lehendakari no pierda este año y mire a toda esa generación ingelesa behar duen eta euskara hezkuntzaren ardatz duen belaunaldi bat da hau

denok izan ditzaten y sí se han hecho otras cosas en ese departamento fotos

ahora posa orgulloso en biocruces que llega gracias a él más tarde más pequeño y más caro ahí en ese departamento tiene un claro ejemplo de cómo perder un año entero los socialistas les dejamos diseñada una estrategia de crónicos y le dejamos diseñado biocruces consultas externas de txagorritxu hospitales de eibar y urduliz y muchas otras estrategias

llevarán la foto del consejero que tanto se opuso a ellos pero llevarán el diseño

y levantemos la vista también con la vivienda la nueva ley entra en vigor pasado mañana

pero le exigimos también lehendakari que defienda esas competencias con la misma contundencia con las que defiende otras porque aquí no se trata de hacer como que se hace que parece que es lo que quiere su gobierno

tenemos competencias exclusivas en vivienda como dice el estatuto tenemos competencias para establecer un canon sobre viviendas vacías como ponemos un canon sobre el uso del agua tenemos competencias para regular el uso de viviendas privadas como pretende su gobierno con las que se destinan a alquileres turísticos si su gobierno cree que sí defiéndalas con todo el énfasis y si la respuesta es que no revise ya todo su discurso grandilocuente sobre el autogobierno porque

mantener los servicios públicos para preservar los derechos de los ciudadanos era y es esencial en medio de una crisis ha contado con la colaboración socialista para hacerlo posible

mirar al futuro ampliar esos derechos en el uso de sus competencias y diseñar estrategias que las hagan seguras sobre todo en las próximas décadas y un futuro también que debe construirse también sobre bases sólidas de memoria y convivencia

y no se construyen diluyendo a eta con otras bandas terroristas eta aún existe lo hemos vuelto a comprobar esta misma semana

las otras bandas terroristas ya no existen y sí son condenadas por todos es importante recordarlo a las víctimas les alivia que se siga trabajando por la verdad y la justicia

le incomoda que detengan a presuntos terroristas no lo olviden las bases sólidas no se construyen

las bases sólidas se construyen sobre principios firmes sobre la ética diciendo claro que matar estuvo mal siempre en todos los casos con esos principios

el memorial de víctimas del terrorismo y hemos puesto en marcha el instituto de la memoria dos iniciativas de la pasada legislatura resultado de un suelo común y de la voluntad de acuerdo

le pedimos que en memoria y reparación trabaje con el método más eficaz que hemos encontrado y donde siempre nos hemos acabado encontrando además

con rigor y con discreción no queremos que esta legislatura pase en balde en esta materia sabe que no abrimos debates estériles pero también sabe que le reprocharemos todos los errores que cometa ambas cosas porque

con casi todo lo que dice pero no con lo que hace su gobierno los socialistas hemos estado en todos los trabajos de memoria porque asumimos con convicción que nadie debió matar secuestrar torturar ni amenazar que no se debió matar ni a un terrorista ni a un torturador porque para ambos debió de existir un juicio

que nadie que murió o resultó herido por excesos policiales puede quedar desamparado por falta de reconocimiento y reparación hay muchas víctimas que siguen esperando nuestra respuesta y tampoco ellas se pueden permitir perder este último año de legislatura hurrengo belaunaldiko euskaldunentzat plan orokor bat

es posible el acuerdo con los socialistas es posible si quiere actualizar el estatuto desde la legalidad y con el máximo consenso que fue el mandato parlamentario

a avanzar por esa línea por eso rechazo el debate de las esencias los socialistas no somos nacionalistas no vamos a asumir los distintos envolvente de las aspiraciones nacionalistas sean derecho a decidir bilateralidad

llame como quiera a nuestra propuesta pero se la puedo explicar muy rápida los socialistas queremos reformar el estatuto para reforzar nuestros derechos sociales y nuestros servicios públicos lo queremos hacer como está previsto legalmente lo queremos en un proyecto colaborativo con el resto de españa

nos podemos encontrar siempre en otros no en la independencia en la autodeterminación y otras reivindicaciones nacionalistas no nos va a encontrar

es su responsabilidad decidir a dónde la quiere llevar y es verdad nuestro estatuto es el único que no está actualizado algo tendrá que ver la pérdida de tiempo en la década pasada ahora se abre ese debate aquí y es inminente la apertura de la reforma constitucional pues bien

una y otra tenemos la oportunidad de hacerlo bien estamos en días agitados pero en euskadi llevamos aprendidas muchas lecciones ya escarmentamos la década pasada

porque los órdagos en política los acaban pagando los ciudadanos sus derechos su prosperidad

de las sociedades a las que pertenecen y haríamos muy bien en no caer en ese juego tenemos un terreno propicio para revisar lo revisable que se llama reforma constitucional y reforma estatutaria

y mediante vías legales nunca ha habido estas circunstancias en euskadi lehendakari si hace treinta y cinco años fue posible entre ruidos de bombas y sables si en estas tres décadas las bombas y los tiros no han conseguido aniquilar aquellos acuerdos ahora el acuerdo también tiene que ser posible

debemos reformar la lth hacer de ella una ley de colaboración y cooperación entre las distintas administraciones vascas hay que clarificar las competencias eliminar las duplicidades

puede parecer teórico poco práctico puede parecer un empeño de este partido pero con mayor eficacia con menos duplicidades se gasta menos en cosas que no necesitan los ciudadanos

al empleo a la economía productiva a atender necesidades sociales reformar esta ley permitirá avanzar en la igualdad de derechos prestaciones y servicios de todos los ciudadanos vascos

del territorio en el que residan y los socialistas ya hemos traído esta propuesta a la cámara esperamos receptividad para trabajarla queremos pensar que todos buscamos esa mayor eficiencia desde la colaboración y el terreno de discusión de la ley municipal

y tenemos que empezar a pensar en una revisión consensuada de nuestro sistema fiscal también hace dos años los socialistas conseguimos desatascar un anatema del pnv hicimos una reforma

queda trabajo todavía que hacer en la lucha contra el fraude en lo acordado pero nos pusimos el dos mil dieciséis como la meta o como la fecha para evaluar esas medidas y abordar otras nuevas y este año

hay mucha tarea lehendakari para las urgencias de este curso y para sentar las bases del futuro euskadi ha girado en estos últimos dos años este parlamento ha impuesto una agenda social a un gobierno paralizado los socialistas hemos provocado ese giro en los presupuestos con propuestas concretas

forzando compensaciones por el repago farmacéutico a las rentas más bajas gestando acuerdos que garantizan por ley el derecho a la vivienda eso es lo que hemos venido haciendo los socialistas

y sentar las bases del empleo del futuro de la sanidad del futuro de la educación del futuro de la administración del futuro eso es lo que necesitamos pero hace falta

necesitamos un gobierno y un lehendakari que garanticen entre los ciudadanos y cohesión entre los territorios un gobierno y un lehendakari que afronten los retos económicos demográficos culturales migratorios tecnológicos necesitamos un gobierno y un lehendakari con un proyecto de convivencia entre vascos

desde el consenso con diálogo y por las vías legales lehendakari usted y su gobierno han demostrado que no tienen respuesta

por eso necesitamos un gobierno y un lehendakari que levanten la mirada más allá de las próximas citas electorales un lehendakari que piense en las próximas generaciones más que en las próximas elecciones un gobierno y un lehendakari ocupados en las necesidades de las personas y sus preocupaciones un gobierno y un lehendakari con capacidad para reparar los graves daños sociales que la crisis ha provocado necesitamos en definitiva

a esa mayoría de ciudadanos que mira el horizonte con incertidumbre lehendakari los vascos no podemos permitirnos el lujo de perder este año
pero tampoco que el país pierda la oportunidad de montarse en el tren del futuro no perdamos este año lehendakari eskerrik asko

eta bakea behin betiko lortuko dugu nuestro compromiso es la garantía de que este proceso es irreversible cuando viajamos por el mundo

cuál es la garantía de que no va a haber un regreso a la violencia y nosotros respondemos nosotras somos la garantía porque si alguien pretende

nuestro compromiso es con la determinación de este pueblo de vivir definitivamente

a diario sin perder una sola oportunidad con el pasado nos amenazan con el pasado como trinchera entre vencedores y vencidos nos amenazan con el pasado

en la disputa partidista nos amenazan con el pasado como muro de contención del independentismo vasco pues aquellos que nos amenazan día a día con el pasado en un vano intento de contener el futuro les décimos que si hoy podemos hablar de pasado es por nosotros y nosotras por lo que nosotros y nosotras hemos hecho y por lo que algunos

continúan estando en prisión es por lo que ellos en este momento pueden hablar de pasado sin embargo

no pueden hablar de pasado porque las violaciones de derechos humanos que sufren son doloroso presente nos gustaría que los que tanto empeño ponen en hablar de lo que ya ha pasado pusieran un poco más de empeño en intentar mejorar el presente de todos esos ciudadanos vascos y vascas dispersadas en cárceles españolas y francesas

hartzen ez duenak betiko nazionalismo baztertzaile espainolarekin bat egiten du quien en este momento no toma partido de forma clara y sin ambigüedades a favor del derecho a decidir libre y democráticamente de los catalanes y catalanas

activamente con el nacionalismo español más excluyente aquel que sufrimos desde el treinta y seis hasta hoy mismo y tomar partido a favor del derecho a decidir en cataluña no se puede ni se debe limitar

exenta de compromisos en este momento histórico donde la determinación del pueblo catalán le lleva

todos los obstáculos y amenazas imaginables a abrir las puertas de la independencia para crear su propio estado este parlamento no se puede ni se debe limitar a ser el primero que reconozca el estado catalán independiente no tengo ni la menor duda un gran honor ser el primer parlamento que reconozca el estado catalán independiente pero en este momento histórico donde el estado español vuelve a mostrar la peor versión de sí mismo tanto en cataluña como en euskal herria nuestra tarea histórica es poner en marcha ya mismo el proceso constituyente vasco

porque poner nuestro propio proceso constituyente en marcha es la mejor aportación que podemos hacer al proceso independentista catalán euskal herria bilduk

busca ser un instrumento legal para hacer a las ciudadanas y ciudadanos vascos protagonistas de las decisiones políticas más importantes en sus vidas por eso la presentaremos en plaza pública para después traerla al parlamento

para la confrontación entre partidos sino una búsqueda honesta de vías para profundizar en la democracia porque honestamente pensamos que la actual democracia

es del todo insuficiente y creemos firmemente que los y las ciudadanas de euskal herria tienen que ser protagonistas de las importantes decisiones que como sociedad tenemos que tomar

maltrato sostenido por parte del estado español a la sociedad vasca y estamos de acuerdo con el partido del gobierno que no hay por qué tolerarlo ni un solo año más la sociedad vasca necesita que sus propias instituciones

por supuesto y eso no es el futuro eso debía ser anteayer esta es la constatación del fracaso de un modelo de relaciones la relación estado comunidad autónoma no funciona y españa no va a dar más nunca va a dar más que sepa este gobierno

cuenta con eh bildu para iniciar cualquier vía que estime oportuna para hacernos con dichas competencias cuánto antes no olvidemos que nosotros al contrario que en cataluña

por lo tanto el dinero está aquí y si nosotros queremos se puede quedar aquí baina iruditzen zaigu askotan gobernu honek burujabetzarik eza

oberts si cal amb els punys tancats per mor

eta ondorio bat una sobre víctimas y violencias

el pleno en lo que llevamos de desarrollo de algunas intervenciones

y yo concluyo que hay quienes no quieren reconocer la existencia de otras víctimas

porque se pretende una memoria parcial de lo que ha ocurrido eta tiene una responsabilidad intransferible

pero aquí han pasado cosas muy graves desde los años sesenta setenta y hasta bien entrado los ochenta y también hay que decir que todavía

no sabemos toda la verdad sobre el gal todavía hay víctimas del gal y del batallón vasco español que no han sido reconocidas

no no señale así el batallón vasco español también tocaba para allá y otras

todavía tienen denegado el derecho a la indemnización eso es real

yo creo que hay que enfrentar esa realidad y esto no es alimentar la teoría del conflicto señor maneiro

es tener una visión integral y también reconocer que el estado de derecho no fue

en muchas ocasiones y eso exige también

y al tiempo que digo eso también hay quienes no quieren analizar y valorar específicamente lo que ha supuesto la violencia de eta

no tienen problema alguno en calificar la violencia del gal

pero eluden el análisis crítico de lo que ha supuesto eta quieren hacer un tótum revolútum en el que se desdibuje todo

eta violó derechos humanos y creo que hoy un compromiso con los derechos humanos es absolutamente incompatible con una mirada olvidadiza de lo que fue vulnerando derechos humanos no es compatible por lo tanto tenemos que superar esas visiones parciales de lo que ha supuesto la violencia y tenemos que incorporar una visión integral

final de la violencia yo me pregunto creen

garantiza de forma segura un desarme total y una desaparición completa de eta yo diría

requiere por parte del gobierno español menos triunfalismo menos unilateralidad y más prudencia

ordenado de la violencia debe garantizar

una desaparición segura y completa de eta no puede haber situaciones

armas fuera de control o militantes fuera de control o una sigla fuera de control esa es la propuesta que una y otra vez

a las instituciones y agentes concernidos y que ha tenido la callada por respuesta en el mejor de los supuestos cuando no el rechazo reflexión o me pregunto se puede gestionar peor

me refiero a la propia izquierda abertzale se puede gestionar peor

se hace desde la autosuficiencia más absoluta y fuera de cualquier sentido de la realidad

después de hace cuatro años todavía eta no tenga un protocolo

de verificación de la autenticidad de esa decisión y esto no lo digo al partido popular me he referido en la primera parte me refiero a quien le corresponda

se puede hacer peor se puede hacer peor sencillamente no se han dado pasos serios efectivos ni en el desarme

del daño causado ni los presos después de aquel anuncio de finales de dos mil trece pues no se dónde ha quedado

manifiesto del colectivo de presos han tenido encima de la mesa siguen teniendo encima de la mesa

también la propuesta de desarme y la propuesta zuzendu yo resumiría en tres frases o en tres conceptos

como es obvio para avanzar hay que dar pasos y hay una referencia que es segura cuando uno tiene dudas tiene que observar qué piensa la sociedad y la sociedad está manifestándose clara e inequívocamente sobre tres definiciones eta debe dar pasos unilateralmente en el desarme y en su desaparición esa es una exigencia mayoritaria el gobierno español

es otra exigencia y creo que las instituciones y los partidos políticos tenemos que construir un proceso de acuerdos

y quiero solamente aderezar con una reflexión porque cada vez que asisto a un acto escucho por parte de los

quiero incorporar una reflexión de presente que también lo que estamos haciendo en el es relato que desde hace cuatro años a ahora ha pasado mucho tiempo y que también es parte del relato lo que son

y digo y añado los posicionamientos o son sinceros

porque si los posicionamientos se producen como consecuencia de la exigencia de un guión

y uno nota por lo tanto yo creo que yo le digo al secretario general de paz y convivencia en muchas ocasiones que tampoco hay que darse más cabezazos que los estrictamente necesarios

no quiere hablar ni de su pasado ni de su presente pues tiene perfecto derecho a hacerlo otra cosa es que después

la confianza que se proyecte a la sociedad sea una u otra entonces hay quien ha determinado

hoy también se ha hecho un planteamiento de principios de presente a futuro

una dificultad extraordinaria esto de calificar el pasado porque a otros también les costó muchísimo tiempo

que desapareció el gal hasta el dos mil tres que todavía había gente en guadalajara hay una partida de años y después con posterioridad la formación política vinculada tomó una posición con respecto al gal al parecer debe ser cuestión de tiempo lo único que quiero subrayar es que las ausencias y carencias en el presente también son relatos son relatos y ahí también nosotros sacamos nuestras propias lecciones y el tiempo dirá

nos hemos referido se ha referido al autogobierno en concreto a los informes remitidos por el gobierno vasco

y que empezamos a hablar de las posibles o teóricas consecuencias y obviamos discutir sobre lo que por ejemplo el portavoz del gobierno vasco dijo

y es la confirmación de que en el informe como no podía ser de otra manera

hay un título competencial referido al régimen económico de la seguridad social

empieza a hablar de lo que pueden ser las consecuencias yo reitero quienes creen en el estatuto de autonomía o dicen creer en el estatuto de autonomía que cumplan que cumplan

que sería la del partido socialista del año ochenta que ya sabemos que prescribió pero claro lo que no pueden hacer es que comulguemos nosotros con su prescripción no y eso es así programa electoral del año ochenta

mesedez isiltasuna la última vez procedimos a la lectura y eguiguren me decía a ver de dónde había sacado ese programa pues bueno ustedes saben de dónde y voy

falaz de que alguien nos está haciendo el favor de no haber transferido porque lo demás esto iba a ser una ruina no yo creo que primero

o a la jubilada vasco o vasca el estado no le regala nada el jubilado vasco no debe a nadie nada su pensión es consecuencia de su cotización

bien nosotros también estamos preocupados por la sostenibilidad pero díganme ustedes porque aquí podemos hacer la acotación de cuando han sido los periodos de superávit

podemos hacer si queremos hacer cuentas empezamos el año ochenta que se tenía que haber producido la transferencia empezamos entonces no
mesedez isiltasuna que solo hable el parlamentario que está en la tribuna por favor y vemos exactamente qué es lo que dan los números yo lo que les digo es que

y de paso si me puede responder a ver dónde es sostenible la seguridad social en qué parte del estado le agradecería porque el déficit acumulado

a la hucha o al fondo de reserva ya se la ha hecho una quita de veinticinco mil y díganme ustedes

descenso acumulado de afiliados a la seguridad social desde el dos mil ocho al dos mil trece

en euskadi cinco puntos menos diez coma cuatro descenso acumulado

es más acusada en españa que aquí cinco puntos si la tasa de empleo en euskadi es mayor que la española en ocho puntos si la tasa de paro en euskadi es notablemente menor en diez puntos por qué regla de tres

me pueden explicar aunque las pensiones aquí sean superiores evidentemente

se cotiza más sabemos en el fondo lo que hay hay un argumento político que ya zapatero lo explicó

aquí no va a haber transferencia y rajoy también dijo aquello de que en la constitución española hablaban de caja única dijo dónde dónde

lo de la caja única entonces aquí hay un miedo

ese vínculo o esa relación con las personas porque es el último vínculo

es el último vínculo sémper sí es el último vínculo desde que una persona

si eso está estatutariamente recogido además y sin materializar por decisión política

sabemos exactamente qué lectura tiene estatus berria bueno

tiene más entradas pero es verdad estatus berriaren

zuen posizioez esaten duzuela queremos un informe sobre el coste económico de la independencia

informes sobre el desarrollo del estatuto y transferencias pendientes nivel de competencias del país vasco tal viabilidad de un sistema de seguridad social

etcétera etcétera piden ustedes los informes y qué responde el gobierno español qué responde

autónoma por lo tanto se deniega la petición o sea ni siquiera tenemos derecho al contraste

no tenemos derecho a pensar no tenemos derecho a pensar se nos niega la posibilidad de pensar

oficiales por parte del ministerio correspondiente eta hor azaltzen zaigu beste gaia

estamos hablando de los anclajes los anclajes evidentemente de la disposición adicional del estatuto de autonomía dice que el pueblo vasco

renuncie a los derechos que le podían corresponder en virtud de su historia

y la adicional de la constitución española dice que ampara y respeta los derechos de los territorios forales que es tanto como decir amparar y respetar es reconocer derechos previos a la propia constitución y no es una cuestión de románticos mire usted no solamente si quiere relacional sabino arana con la foralidad en bizkaia pues tiene aquí a mateo moraza en álava mire a arturo campión en navarra

raíz foral en los territorios de iparralde léase la alternativa garat de los tiempos de napoleón

estamos hablando de derechos históricos de los territorios vascos